muchas gracias señora presidenta como todos ustedes saben la legislatura pasada

este pleno de esta cámara aprobó una enmienda transaccional por unanimidad

que estudie dos digamos que zonas del país vasco que se caracterizan por tener unos indicadores socioeconómicos

se aprobó por unanimidad se ha trabajado durante la legislatura pasada y durante esta legislatura ha habido más de treinta y cinco comparecencias cada uno de los comparecientes de la margen izquierda del gobierno de los gobiernos de las administraciones de los ayuntamientos

un poco por el principio leyendo cuáles son esos indicadores negativos de estas dos zonas de la margen izquierda zona minera y oarsoaldea y podemos decir que esos indicadores negativos

son uno población envejecida el primer puesto en el índice de envejecimiento vegetativo negativo alta tasa de desempleo más del veinte por ciento el doble que el resto de la comunidad autónoma con el agravante de la

alta tasa de fracaso escolar hasta el treinta por ciento en ezkerraldea

en los últimos años alta densidad demográfica

están a la cola de la comunidad autónoma en nivel de formación secundaria y terciaria

especialización en trabajos de poco valor añadido

lo que lógicamente provoca un nivel tecnológico inferior con respecto a otras comarcas o zonas bajos niveles de internalización de las empresas que trabajan en esas zonas lo que conlleva poca capacidad exportadora progresiva degradación urbana y por lo tanto degradación social incremento de la tasa de pobreza real y de las ayudas sociales como

según se incrementa la pobreza se incrementan las ayudas sociales y un gasto inversión municipal bajo debido principalmente a la alta dependencia

ingresos que después repercutan en mejorar los servicios bueno estas son las conclusiones de los índices a los que hemos llegado en la ponencia

y esta ponencia ha llegado a unas conclusiones

pese a otros planes anteriores al menos dos interinstitucionales y a las inversiones realizadas por las diferentes administraciones

y esas políticas impulsadas por el resultado es evidente que ha sido insuficiente no se han corregido

y se ha llegado a dos tipos de actuaciones o recomendaciones que es lo que puede hacer la ponencia porque es evidente que la ponencia no gobierna ni es administración ni puede ni puede

por sí misma y hemos llegado a dos tipos de recomendaciones una que tiene que ser inmediata con el planteamiento de que se ponga en marcha en el plazo de tres meses un plan de choque que atienda prioritariamente las peticiones de los ayuntamientos un plan de formación laboral

que se incrementen las inversiones que se realizan digamos que esto sería como urgente en ese plan de choque y luego por supuesto un plan estratégico

como son evidentemente los ayuntamientos las diputaciones el gobierno vasco el gobierno central y la unión europea además de agentes económicos y sociales

y yo como no quiero tampoco quitarles al resto de los compañeros de la ponencia los planteamientos que

como tenemos un acuerdo unánime pues esperemos que este plan o estas conclusiones de esta ponencia

lo que instamos en este caso al gobierno vasco que es el que está sentado hoy aquí es el que se ponga en marcha y tire del carro
plan interinstitucional pues al final sea una realidad y funcione eskerrik asko damborenea jauna

egun on guztioi bienvenidos a los alcaldes y alcaldesas de la margen izquierda y de meatzaldea

aprobamos por fin un proyecto cargado de futuro para la ciudadanía de cuatro comarcas que estaban esperando respuestas

por unanimidad de esta cámara en esta cámara demostramos que como vinimos insistiendo los socialistas nuestra agenda debe ser

tienen que ser las suyas y para mi grupo un acuerdo como el de hoy solamente por eso pero además lo tiene porque en las respuestas que acordamos hemos puesto en línea a todos los agentes sociales y a todos los niveles institucionales ayuntamientos diputaciones gobierno vasco y gobierno de españa y si algo debemos de tener en cuenta y a mi grupo no se le olvida es que las grandes transformaciones que hemos visto en euskadi han requerido siempre de ese esfuerzo conjunto

recordamos que sin esa colaboración interinstitucional no habría sido posible el bilbao y el barakaldo que hoy conocemos ni en urbanismo ni en vivienda ni en transportes ni en medioambientes o en turismo para los socialistas acuerdo de hoy recoge ese mismo espíritu y lo hace además teniendo muy presentes las aportaciones de todas las personas que han querido participar en esta ponencia y entre ellas me van a permitir acordarme de un sociólogo reconocido como uno de los mayores expertos

me refiero a víctor urrutia porque desgraciadamente para él

a la apuesta por estas comarcas y también como socialistas queremos destacar ese esfuerzo realizado un esfuerzo que les decía tiene su reflejo

su iniciativa que sabe que desde el minuto cero tuvo el apoyo de los socialistas y su plena implicación y agradezco la labor de consenso final

no haré una mirada retrospectiva de las comarcas porque es de sobra conocida y en este parlamento además se ha realizado en diversas ocasiones porque yo creo que hoy la mirada tiene que estar

ha habido determinados elementos que se han puesto de manifiesto con mayor intensidad durante los trabajos de la ponencia y que establecemos en el desarrollo de las conclusiones como un eje transversal en el desarrollo de los dos instrumentos que hemos considerado

el plan de choque y el plan interinstitucional unos instrumentos que deben de partir desde la necesidad de un acuerdo de mínimos sobre un diagnóstico compartido

social y económica que se deben de implantar en estas comarcas la perspectiva de la comarca ha de ser completa y debe de girar tanto en torno al territorio como a las personas como a la economía el plan de choque

al que se le fijan tres meses para su elaboración y que deberá contener entre otras cuestiones una que resulta fundamental un plan para la formación y para la integración laboral porque uno de los mayores retos a los que se enfrenta esta comarca es la baja o la inadecuada formación de los desempleados o las desempleadas que hay en estas zonas un plan que partiendo desde un estudio de la recualificación para la reinserción en el mercado laboral

para una adecuada unión de la oferta y de la demanda de los perfiles profesionales para que haya un fluido tránsito entre la etapa educativa y la laboral

y una mejor orientación de la formación hacia los sectores estratégicos apuntamos para ello un instrumento de gestión que para los socialistas es imprescindible la creación de un centro de formación integral en cada comarca que desde la implicación y la colaboración de todos los agentes implicados y en esto nos referimos tanto a las instituciones como a los centros formativos a los sindicatos y a los empresarios analice diseñe

tanto a desempleados como a trabajadores para la ejecución y el desarrollo de este plan de formación como no puede ser de otra manera se propone la creación lógicamente de un fondo especial

que debe asumirse por todas las instituciones competentes en esta materia ayuntamientos diputaciones y gobierno para que el esfuerzo que hay que realizar también sea un esfuerzo compartido y por supuesto los socialistas también compartimos con el resto de los grupos que el plan estratégico

debe desde una perspectiva de comarca realizarse superando visiones más localistas

han de implantarse para corregir los desequilibrios y desigualdades que se sufren en estas zonas un plan

personas y economía territorio desde la óptica del parque de vivienda de los instrumentos de planeamiento de las mejoras medioambientales de la cohesión del territorio a través del transporte y de las infraestructuras unas políticas que prioricen y unas acciones políticas de regeneración urbana que mejoren el atractivo

y que desarrolle infraestructuras desde ópticas más saludables y sostenibles también desde el eje de las personas

la inclusión y los servicios sociales y comunitarios hay que centrar nuestros esfuerzos en atajar la alta tasa de fracaso escolar desde la concertación de acciones con la comunidad

oportunidad de cohesión social intergeneracional y también desde la economía lógicamente para atraer proyectos industriales establecer un plan de apoyo

apoyar a las empresas existentes para su consolidación y mejora de actividad

de algo importante también y que ha sido marcado por todos al intervenir que es ese potencial turístico que está vinculado al pasado industrial que es la auténtica seña de identidad por ejemplo

en fin muchas y diversas líneas de actuación muchos y diversos agentes implicados

y lo vamos a aprobar por unanimidad sí pero no acaba aquí nuestro trabajo queda ahora un recorrido para exponer y para comprometer a todas las partes un trabajo que desde la ponencia

hoy del dictamen finalizo mi intervención agradeciendo a todos la participación y los esfuerzos realizados

ambicioso con carácter o con espíritu si no vinculante sí vinculador para el resto de las administraciones que tienen que jugar un papel fundamental en el desarrollo de estas comarcas como son ayuntamientos las diputaciones el propio gobierno del estado y también la unión europea pero bueno esperamos que sirva este documento de conclusiones y recomendaciones

nuestras aportaciones cincuenta y uno como había comentado sí que es verdad que algunas están dentro otras quedan más desdibujadas pero ha sido un

nosotros y nosotras estábamos abogando más allá de identificar los sectores estratégicos a los que teníamos que dirigir la economía de estas comarcas por una intervención pública muchísimo más directa sí que es verdad que se hace un reconocimiento a la necesidad que desde los poderes públicos se identifique los sectores

en ese sentido y por tanto por ahí va la aportación que habíamos hecho y que hemos consensuado entre todos los grupos una aportación fundamental y que queda recogida y que nos parece fundamental era un diagnóstico independiente de las políticas que se habían realizado hasta ahora porque

surtido el efecto que se esperaba por tanto ese diagnostico está ahí y como la evaluación

ese control por parte del parlamento también la

institucional que la señora castelo ha citado nosotros habíamos propuesto que se creasen autoridades específicas y especiales para la gestión de estos planes bueno todavía no

en esa fase pero creo que la coordinación institucional queda suficientemente reflejada en el documento de conclusiones y esperemos

que así sea el plan de choque y plan estratégico ya ha sido

castelo nuestras propuestas iban más allá de lo que está en el documento pero queda claro que la apuesta tiene que ser por la reconversión de los sectores

de alto valor añadido en sectores industriales de alta tecnología por la economía verde que queda bien reflejado en la apuesta por la transición energética

que nos ha faltado cierta ambición para afrontar un reto que tenemos que es la dependencia del gas que tenemos en el puerto de bilbao y

uno de los elementos de la comarca de ezkerraldea y meatzaldea y también del futuro de la planta de

tractoras de la economía como son la naval que sabemos cómo está en estos momentos

seguiremos trabajando también en ello en cuanto a la educación ha sido mencionado también hasta ahora el estudio y el combate al fracaso escolar desde un ámbito que queda reflejado en el ámbito socio educativo porque no solo es desde el ámbito de la educación y exactamente lo mismo para la formación profesional y el trabajo específico que tiene que hacer lanbide en estas comarcas con planes

otros sectores de la economía que son fundamentales para el desarrollo de estas comarcas como el de la regeneración

no solo como fuente de trabajo sino como fuente de dignidad de la vida de las personas que habitan en estas comarcas y en el conjunto de nuestro país

de la vivienda va en ese sentido un tema fundamental que

está reflejada y también el sentimiento de pertenencia a estar comarcas que no solo se logra con campañas sino que se logra con políticas públicas pero también con campañas que resalten el sentimiento de pertenencia a ezkerralde a meatzaldea

y el envejecimiento de estas comarcas también especialmente resaltar la aportación que únicamente había hecho nuestro grupo y queda reflejado que es la transversalización de las políticas de igualdad tanto para los planes de choque como para los planes interinstitucionales y pensamos que eso es

y voy concluyendo como empezaba evidentemente no es el documento que elkarrekin podemos hubiera aprobado pero estamos muy satisfechas de que es un documento de consenso es un documento positivo que esperamos que sea un documento que sirva para hacer un trabajo serio

en los del año pasado nuestro grupo presentó planes de choques específicos para estas comarcas que fueron rechazados esperemos que este año tanto en el gobierno vasco como en diputaciones y ayuntamientos se haga

tan necesario porque ojalá no volvamos a oír aquello de

perdida la ilusión los problemas continúan sin hallarse solución

paso que damos hoy que esta aprobación del día de hoy sea el fin de esas palabras eskerrik asko

enpresa acb la naval productos tubulares

con el tratamiento que se le ha dado desde las instituciones a estos eskualdes en los últimos años

enfatizar las diferencias y las críticas pero creo que debe mencionarse hablábamos de una deuda histórica y esa deuda histórica hasta ahora no ha sido satisfecha

de planes que trataron de paliar precisamente la desaparición del modelo productivo tradicional en estas comarcas podemos discrepar

o mal enfocados pero entorno a lo cual hay un consenso es a que esos planes no han sido suficientes y por tanto

nuevas aportaciones en esa dirección y precisamente

es la aportación que hacemos desde este parlamento a la construcción al diseño y a la apuesta por un nuevo modelo productivo para la margen izquierda

creo que esos cuatro son los grandes ejes sobre los que pivota esta aportación que hacemos desde el parlamento

nuevo modelo productivo compromiso interinstitucional y participación social

a la problemática de unas comarcas que realmente están a la cola

socioeconómicos en este país entendemos que es importante y por eso no voy a hacer hoy mención de propuestas concretas

entendemos que es importante el articular un proceso de participación para que sea el conjunto de los agentes socioeconómicos de las comarcas implicadas los que puedan

porque no se trata solo de compartir un análisis sino que se trata de emplazar también a esos agentes a que sean protagonistas de la solución porque apostamos por el desarrollo endógeno y el desarrollo endógeno no se puede sin la aportación sin la participación y sin el protagonismo de los agentes implicados antes se hacía mención a una canción de eskorbuto yo voy a mencionar también a la polla records para no ser menos cuando decía

es verdad que hay cosas que han cambiado en estos eskualdes en estos eskualdes las fábricas y las casas ya no están entremezcladas en un continuo

bastante difícil han quedado huecos y en esos huecos se han construidos nuevas viviendas

incluso algún parque se ha lavado la cara a la margen izquierda a la zona minera y a oarsoaldea se puede colgar la ropa en los balcones sin recogerla

o de las partículas de acero que emitían la multitud de fábricas que como decía estaban entreveradas

pero seguimos teniendo un problema estructural seguimos careciendo de un modelo productivo que vertebre la actividad socioeconómica de estas comarcas y permita a los cientos de miles de personas que viven en ellas tener un futuro digno y tener empleos y vidas

alkate jaun andreei egun on eta berriro ongietorriak en primer lugar me gustaría poner en valor el trabajo realizado durante

el consenso alcanzado en esta ponencia no me atrevería a decir que nunca pero pocas veces hasta ahora nos habíamos puesto de acuerdo todos los grupos políticos sobre una problemática que se arrastra desde la década de los años ochenta del siglo pasado fruto principalmente de la fuerte desindustrialización de estas zonas lo que consideramos muy positivo

hemos sido capaces todos los grupos parlamentarios de consensuar unas conclusiones y unas recomendaciones

esta problemática en cuanto a metodología inicialmente se nos planteaban dudas

para oarsoaldea al final hemos optado por hacer un plan marco para zonas desfavorecidas que incluso

a futuro las conclusiones han sido compartidas por casi todas las personas comparecientes y están basadas en datos objetivos a pesar de contar con una situación geográfica inmejorable de estar dotados con importantes infraestructuras y de todas las políticas impulsadas en las últimas décadas por las administraciones orientadas a la mejora de la situación de las personas

que se constatan a través de una serie de indicadores negativos que demuestran la situación real actual de las zonas objeto de análisis que el señor damborenea ha mencionado en conclusión nos encontramos ante los entornos más desfavorecidos de la comunidad autónoma vasca tal y como también lo ha declarado la unión europea sin olvidar enkarterri

desde todas las instituciones para tratar de frenar e invertir definitivamente la tendencia de esta situación beraz ezkerraldea

son zonas donde se demandan importantes procesos de regeneración urbana económica y social

un acuerdo de mínimos en cuanto a la visión compartida sobre el diagnóstico y sobre todo

eta eskualde planteamendu horretatik abiatuta beharrezkoa iruditzen zaigu bi jarduera mota egitea que se ha mencionado antes un plan de choque para atender de manera urgente

y en el plazo de un año un plan estratégico interinstitucional de reactivación socioeconómica plan participativo con las instituciones respetando lógicamente sus ámbitos institucionales y donde tengan cabida los agentes económicos o sociales y trasversal creo que es un matiz que ha quedado un poco voy a hacer hincapié en él

también es necesario adoptar medidas en materia de políticas sociales educación formación vivienda

patrimonio infraestructuras turismo comercio transporte medioambiente cultura etcétera etcétera

bajo el epígrafe de recomendaciones se han elaborado una serie de directrices y objetivos mínimos a tomar en consideración en el diseño de estos planes estratégicos interinstitucionales que podríamos resumir en los siguientes puntos tal y como decíamos antes sobre la trasversalidad

con una perspectiva completa y abarcar los principales aspectos socioeconómicos en segundo lugar es fundamental la necesidad de formación como eje de futuro apostando por la cualificación y la recualificación de colectivos con mayores dificultades de inserción la formación dual

tercer lugar uno de los ejes principales como decíamos debe ser la reindustrialización continuando con la apuesta

y con el trabajo para la atracción e implantación de nuevas industrias

o ayer mismo la presentación en el puerto de bilbao de la empresa de energía eólica

para hacerlas más competitivas y promover su internacionalización también en cuarto lugar se ha mencionado aquí promover su indiscutible potencial turístico y el comercio y finalmente

más amables y amigables eliminando la infravivienda y regenerando zonas degradadas desarrollando

y fomentando las líneas de política pública de alquiler para jóvenes y de oferta pública de vivienda como pueden observar muchas de estas propuestas ya se están llevando a cabo ayuntamientos diputaciones gobierno vasco siguen trabajando porque son conscientes de la realidad que se vive en estas comarcas a pesar de las críticas

creo que ya está en marcha un plan director consensuado por todas las partes en ellas implicadas para llevarlo a cabo se necesitan básicamente tres ingredientes en primer lugar voluntad política

hoy demostramos aquí que la compartimos en este momento y ahora todos los grupos parlamentarios y con el valor añadido de que además todos estos grupos parlamentarios aquí presentes tenemos representación en todos los ámbitos institucionales aludidos en segundo lugar el tiempo las medidas del plan entendemos que deben ser sostenidas en el tiempo y en tercer lugar los recursos económicos

instituciones por lo tanto esa voluntad política va a exigir más sacrificio y esfuerzo a las instituciones pero también debe ser compartido por todos los grupos políticos que hoy apoyamos este plan y mostrar el mismo apoyo cuando sea necesario quisiera finalizar mi intervención cómo no agradeciendo a todas las personas

aportando su punto de vista y sus propuestas de mejora en esta ponencia parlamentaria que se ha dilatado en el tiempo pero que esperamos que su resultado sea productivo y marque

presidenta consejera consejeros señoras y señores parlamentarios bien

que con esto de que se ha quitado el segundo punto del orden del día seguramente que se repartirá pero bueno los portavoces

el acuerdo al que hemos llegado así que y es unánime así que en ese sentido yo creo que se ha encarrilado bien este debate

interpelábamos al consejero de cultura y política lingüística en el último pleno en relación con el apoyo y fomento

con alguna identificación de planes y de programas que

los empresarios quienes trabajan en el mundo del libro pues habían identificado como necesario hemos llegado a un acuerdo voy a ser breve porque yo creo que lo fundamental es entender que hay que que el gobierno tiene trabajo en relación con la elaboración de un plan

de la lectura y del libro y en ese sentido hemos llegado al acuerdo de instar al departamento de cultura y política lingüística del gobierno vasco a que elabore y presente en este parlamento y a la sociedad un plan de apoyo y fomento a la lectura y el libro

lógicamente en lo que son los elementos claves de ese plan de lectura

de hábitos de lectura consumos de libros que tenga como fundamento porque el señor consejero hablaba de trece aspectos en relación con la incidencia del fomento de la lectura

en su intervención del once de mayo de dos mil dieciocho hablaba de esas trece directrices trece aspectos que influían que nos parecía interesante

general además de esos trece aspectos seguramente habrá algunos otros más

clave de un plan de apoyo a la lectura y al libro también décimos en la enmienda de transacción que

tiene que ser un contenido general abierto a todo lo que es analizar cuál es la situación de la lectura la situación del libro la identificación de los problemas

cultural en ese ámbito y luego tomar medidas pero hay algunas cuestiones que sí que necesitan seguramente un trabajo especial y por eso mismo décimos y a propuesta además de los grupos parlamentarios que han emendado

original la moción que este parlamentario presentaba de una manera absolutamente constructiva lo cual ha facilitado mucho el acuerdo pues también se decía y se especificaba que en el contenido del plan

el impulso a una oferta de contenidos atractiva y de calidad a todos los segmentos de la ciudadanía vasca

elemento fundamental nosotros fundamentábamos la interpelación al señor consejero en un documento también en un plan de fomento de libro y la lectura que

de artes gráficas especializadas en la producción de libros había elaborado o sea que en ese sentido

privada o que los libreros y las personas que se dedican a ese mundo de la lectura pues trabajan con lo que es la iniciativa pública y en ese sentido

esa participación que tiene que ser del plan con la gente que conoce también ese mundo es decir además sabemos que hay una conexión sabemos que efectivamente

recientemente también reunidos con la cámara del libro y hemos visto que bueno que lo bueno

entre las instituciones públicas y estas iniciativas privadas que desde luego son esenciales en una actividad cultural que es quizás sea la más potente la del libro la de la lectura porque abarca desde luego todos los órdenes de la vida como recordábamos el otro día el cultural el educativo el profesional o sea que en ese sentido yo creo que está esa participación del sector es importante pero también es importante como hemos reconocido el impulso a la lectura en euskera

editado en euskera y aquí en el país vasco el fomento de la labor social de dinamización de la lectura como se recordaba así como

la garantía de los derechos de la personas con dificultades para leer y escribir es decir hay que también

y desde luego pues como recordaba el refuerzo de los servicios y recursos de la red de bibliotecas de euskadi como servicios más cercanos

que están ahí como decía el plan

que había redactado la cámara del libro de euskadi decía que ponía ese plan suyo desde su ámbito a disposición de la sociedad en el país vasco y

lo recogimos en la interpelación que planteamos al señor consejero y ahora la cámara lo recoge instando al gobierno a

fundamentado también en actuaciones las cosas se hacen efectivamente los presupuestos hay presupuestos para el fomento de la lectura hay presupuestos para el fomento de las editoriales o de la producción literaria ahora vamos a hacer un plan que desde luego dé forma a

hay nuevos paradigmas en relación a la lectura y al libro no solo la

aspectos que hábitos de consumo es decir hay unos cambios sociales y culturales

evaluarlas es bueno verlas para seguir fomentando la lectura es el elemento básico de la cultura en desde luego en nuestra sociedad y ese es y la generación de esos hábitos de lectura hay que seguir

con la compra del libro con el consumo de libros con el fomento del comercio del libro con el apoyo

es decir está ahí hay cosas claro que sí hay cosas aparte de las iniciativas privadas

de euskadi ubicado en la educación lógicamente el plan del que hablamos tiene que ser un plan dirigido al conjunto de la sociedad hay informes importantes del sector del libro

a nivel estatal pero bueno nosotros tenemos que hacer también un trabajo tenemos cuestiones por las que andar el otro día el consejero hablaba y por eso mismo

dentro de la iniciativa de la moción importancia a una serie de aspectos a una serie de directrices seguramente

se enmarcaba aparte de la educación del sistema educativo a parte del adiestramiento por ejemplo

del profesorado pues están otras muchas cuestiones que tienen que ser con la importancia de los contenidos digitales con el apoyo literatura gráfica un elemento muy importante el apoyo a escritores la creación y la edición bueno eso ya lo hemos dicho forma parte de las prioridades los premios literarios de euskadi el apoyo esencial a las ferias a lo largo de nuestra geografía hay ferias en torno al libro y a la lectura y desde luego es bueno mantenerlas orientarlas y estimularlas y apoyarlas

el análisis de los mercados exteriores y cómo nos afectan y las herramientas que se han puesto en marcha durante todos estos años

vasca y desde luego todo esto enmarcado en un análisis permanente es decir que

sea algo activo algo vivo algo que no muera simplemente con un plan

sea un plan de continuidad de todo ello es decir en el documento

lo que se denominó la cámara del libro de euskadi el plan vasco del fomento

muchas iniciativas muchas medidas de apoyo del libro y la lectura medidas de apoyo al fomento de la lectura hablaba también de otras que escapan del ámbito fiscal por ejemplo medidas de apoyo a la edición en el ámbito de la propiedad intelectual medidas antipiratería lógicamente

otras instituciones medidas a la producción y comercialización medidas de apoyo a la librerías es decir se puede hacer mucho se puede trabajar

que el gobierno está dispuesto a abordar este análisis un plan de fomento y de apoyo al libro y a la lectura es necesario lo ha constatado la sociedad y los expertos y en este sentido pues estamos

de dos puntos ha sido fácil el acuerdo y yo agradezco al resto de grupos su aportación

a este acuerdo en favor del elemento cultural clave en nuestra sociedad que es la lectura y el libro muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

hoy nos toca debatir en torno a una propuesta del grupo popular sobre los hábitos de lectura y la necesidad existente para que desde el departamento de cultura y política lingüística se elabore un plan con el fin de fomentar y apoyar la lectura

en nuestra comunidad un plan estratégico que garantice por igual el acceso a la cultura a toda la ciudadanía ante una nueva realidad y que se adapte

y demandas existentes los cambios sociales y culturales en los que se halla inmersa la sociedad vasca actual nos dibujan una nueva realidad

a la distribución y a la venta de libros sino que también al perfil del usuario cultural con unos nuevos hábitos y formas de consumir cultura para afrontar

entendemos la necesidad y urgencia de un plan de fomento del libro y de la lectura que sea capaz de asentar las bases desde la colaboración departamental y la coordinación institucional para que seamos una sociedad formada

en sus diferentes formas de expresión es fundamental que en dicho plan colaboren y participen los diferentes agentes del sector del libro

y distribuidoras hasta libreras bibliotecarias y creadoras con el objetivo de aumentar los hábitos de lectura y fortalecer nuevos canales de comercialización y de consumo que supongan un incremento en el número de lectoras en euskadi la lectura es una herramienta básica en el aprendizaje y la formación integral de las personas es una de las piedras angulares para la adquisición de conocimientos leer la lectura es una de las mejores habilidades que podemos adquirir ella

y permitir que adquiramos conocimiento y que entendamos el mundo y todo lo que nos rodea también que podamos viajar a cualquier sitio

o que podamos ser la persona que queramos ser por un momento y es que leer nos abre puertas nos abre las puertas del conocimiento

todo lo que nos rodea es lectura leer es comunicación es esencial para estar conectado al mundo y a las personas sin la lectura no conoceríamos no tendríamos información y nos costaría más imaginar la lectura

la lectura nos mantiene vivos y conectados nos hace libres y podemos sentir sus beneficios de múltiples

maría moliner en mil novecientos treinta y siete mediante una carta

hablaba de la capacidad de mejoramiento espiritual de las personas a través del fomento de la lectura y no le faltaba razón

esos mismos hábitos tenían un efecto tan saludable a la mente como en el físico un estudio realizado en la universidad de yale durante doce años a personas de más de cincuenta años llevó a la conclusión

daba una ventaja de supervivencia sustancial respecto a los que no lo hacían

más de tres horas y media de lectura a la semana otorgaban un veintitrés por ciento menos de posibilidades de morir argumento de peso para tomarse en serio lo de abrir un libro hay experimentos

de aquello que contienen las páginas quien más lee genera más conexiones porque tiene un mayor número de experiencias virtuales los contenidos de las páginas no dejan de ser

le servirán para detectar y resolver más fácilmente un conflicto para aumentar la empatía y para sobre todo rellenarnos

de construir nuevas alternativas vitales para transformar nuestra sensibilidad y pensamiento ciertamente no hay herramienta más adecuada que la lectura por todo ello

que el futuro plan de apoyo y fomento de la lectura y el libro ha de tener como principal objetivo el incremento de la demanda lectora mediante la promoción extensión y consolidación del hábito de la lectura el libro constituye una herramienta imprescindible

para dotar a las ciudadanas de recursos necesarios para su desarrollo personal

e incrementar su capacidad de reflexión compresión y crítica

leer nos hace más libres por eso valoramos de forma positiva haber conseguido el consenso de esta cámara con la enmienda de transacción que hemos firmado para que el departamento que dirige el señor zupiria presente un plan

en nuestra comunidad centre los ejes estratégicos sobre los que bascula las transformaciones que vive el sector del libro y

líneas de actuación que orientes las políticas que incidan al sector desde perspectivas diversas y complementarias

o las industriales para ello es importante que para dotarlo de recursos se incluya su financiación y así lo especifica la enmienda

así como la de todos los elementos que integran el plan de las trece directrices como ejes fundamentales de este plan

el pasado once de mayo en el pleno de control destacamos varias cuestiones para elkarrekin podemos dentro de este plan es importante el papel de las bibliotecas

de la red de bibliotecas de manera coordinada con su tejido social de proximidad incluyendo la actualización de fondos y ampliación de contenidos digitales la renovación tecnológica

o la diversificación de los programas de actividades culturales y de mediación además hay que impulsar medidas que propicien la coordinación en la red

como la creación de una plataforma pública de código abierto de prestamo de libros electrónicos y la creación de un carnet único para toda la red de bibliotecas públicas de euskadi por otro lado también creemos que hay que tener en cuenta

de este eslabón fundamental de la cadena de valor del libro crucial en el trato con el lector y en la conversación de la diversidad editorial frente a la tendencia monopolística de las grandes plataformas digitales apoyar al pequeño comercio local con la apertura y realojo de librerías incentivos para la inversión la modernización del sector

las ventas a instituciones públicas incluir también espacios de lectura fácil en todas las bibliotecas públicas para facilitar el acceso a la lectura

y los libros en euskadi el mundo del libro y de la lectura es un sector muy feminizado

que reflejan que la presencia de mujeres es de hasta un diez por ciento mayor

una vez más el ochenta por ciento de los altos cargos empresariales son masculinos hay que eliminar la brecha exigiendo transparencia salarial e igualdad en el acceso a los cargos de responsabilidad así como la participación igualitaria en las plataformas

puesto que las mujeres solo ganan por ejemplo el veinte por ciento de los premios literarios dentro de la precarización del sector en momentos de bache de las mujeres

se licencian más que ellos y entran a trabajar en condiciones peores es una profesión

los jóvenes son más mujeres y están peor pagadas que antes hay que contar para ello con los diferentes colectivos que trabajan para erradicar la desigualdad en el sector del libro como señalar por ejemplo eventos ferias y festivales donde no hay mujeres ni autoras ni entrevistadoras y se dé por supuesto

las autoras por todo ello y en definitiva la cultura y la lectura son un derecho que tenemos que garantizar a todas las personas

el plan en los próximos meses para que en euskadi la lectura y el libro sean herramientas educativas y de aprendizaje que nos lleven a la inclusión la cohesión social la información y

y se apoye y fomente su acceso creación distribución y consumo para fortalecer de esta manera nuestra diversidad social

decía que impulsar la lectura es un compromiso político pero también personal muy personal y como decía el otro día en una entrevista joseba sarrionandia
acuestate con un buen libro y si no con alguien que lo haya leído eskerrik asko

señora presidenta pues sí comparto la cita que mencionaba la señora agirre y además parte de la crítica pero no solo falta el gobierno también muchos y muchas

el hábito de la lectura y la lectura sino en general como compartirán muchas de las personas que comparten conmigo comisión la cultura en general a pesar de lo que luego salga en los sociómetros no voy a repetir

ha sido común el hecho de que pidamos un plan un plan creo que también lo decía la portavoz de podemos que responda a todos esos cambios

que incida en esos nuevos hábitos de consumo de la lectura dentro de todas las actuaciones que sabemos que debe atender un plan de fomento de la lectura se habla y se habló

y que afecta a la librería al librero darles apoyo se habla también del fomento de la lectura en la educación

en nuestras casas y del fomento de la lectura en las fuerzas políticas a las que pertenecemos dando importancia a un

también referimos dentro de la enmienda transaccional esos nuevos paradigmas y los vértices que se han señalado escuela

hay que cumplir exquisitamente las normas educativas para llevar a la lectura diaria

en las escuelas vascas las bibliotecas

de las bibliotecas vascas y además posibilitarla en aquellos municipios más pequeños que no tienen

de recursos y por fin tenemos que hacer referencia a la nube claro que sí haremos referencia a la nube pero no dejemos de hacer referencia como decía la señora

a la educación de los padres de las madres de los primos de los amigos de las amigas para fomentar la lectura

queremos un plan vasco luego se desarrollará todos y todas tendremos la oportunidad de estudiarlo y

paradigmas pero permítanme a mí que señale algunas de las cuestiones que como socialista en representación del grupo socialista quiero

no solo debe ponerse en el plan lector debe cumplirse en los colegios y en las ikastolas el cumplimiento de las normas educativas que establecen la obligación de la lectura diaria del impulso de la lectura diaria en ambas lenguas y también

vasca también el acceso

el acceso para los niños y niñas de nuestro país debe ser igualitario en todos los municipios sean más o menos pequeños y en las dos

la portavoz de podemos de la ciudadanía en igualdad a los libros

luego hablamos y esperamos que trate ese plan medidas trasversales de apoyo al sector del libro de apoyo a la edición de libro y de apoyo a la propiedad intelectual a su protección y también a las librerías y ahí permítanme también hacer

esos centros de formación y de consulta tan importantes siempre pero también tenemos que trabajar

concepto de librería como espacio cultural de visión de la cultura de accesibilidad cultural de primer orden que llegue no solo a algunos

nuestros jóvenes nuestras jóvenes y donde están todas aquellas personas que les ha costado acercarse al libro y al hábito de la lectura no es solo un espacio económico una librería

se convierte en un elemento cercano a la ciudadanía para conseguir visibilizar y compartir esa cultura no solo se va a vender libros se va a compartir

los clientes las clientas que hay allí los propios autores ahora

apoyar económicamente a aquellas que pasan dificultades que también

adolfo lópez chocarro en el diario vasco el librero

la plaza de gipuzkoa en san sebastián a reyes católicos que es un lugar de movimiento de mucha

joven y la verdad es que él resaltaba ese hecho de que se estaban encontrando con un espacio que a lo mejor no era tan accesible en medio de un lugar en el que sí se mueve

sino que se conocen se comparten y se aprenden a disfrutar los libros

muchas personas dicen de esta sociedad está sobre estimulada tenemos ipad

chorras de televisión con permiso de todos y todas los hay o la llamada tele basura y luego tenemos el móvil que parece una tienda de suvenir hay de todo soy una de las que lo utiliza desde el whatsapp a facebook a twitter

multimedia de verdad pensáis que los niños y las niñas nuestros jóvenes ven atractivo leer pues por desgracia no

de ser niños cómo quiere cómo queremos me voy a incluir que nuestros hijos lean si no nos han visto nunca con un libro

si queremos un futuro con personas que tengan un nivel cultural razonable

de tener ideas propias de argumentar de persuadir de ser imaginativos que tengan pensamiento propio por favor fomentemos la lectura tanto

de educar no solo en valores sino en conductas sanas para nuestros niños

contra esos avances tecnológicos creo que cada uno tiene su función dentro de la sociedad actual que ahora disfrutamos

ninguno puede suplir los beneficios de la lectura los libros ayudan al cambio de actitudes a soñar a viajar

porque también hay libros que hacen reír la lectura también está relacionada con la confianza la autoestima y la seguridad

porque aporta seguridad mejora las relaciones y es una fuente de bienestar

por tanto aparte de ese plan que comparto y del acuerdo logrado que agradezco la iniciativa del señor barrio y luego las aportaciones y la

además de eso para enganchar a niños y mayores a la lectura hablemos de la lectura en términos positivos

o del amor inculquemos el hábito de leer siempre y sobre todo hagamos nosotros y nosotras el esfuerzo de leer

que entrar en una casa y no ver un libro a mí estas casas me deprimen personalmente es una de las primeras cosas en las que me fijo y además tiendo en seguida cuando veo libros

me encantan las casas con libros y me encantan los sitios que dan lugar

porque me encanta la lectura y todo lo que me da la lectura gracias eskerrik asko romero andrea euzko abertzaleak ramírez escudero jauna zurea da hitza

behar dira cuando hablamos de lectura se debe entender que no hablamos simplemente de la función sana intelectual

sino que también estamos hablando de todo lo que hay detrás del libro es decir del empleo que genera el libro de las empresas que están detrás los derechos del autor del diseñador

en euskadi es decir que no solo hablamos de lo bonito que es leer y lo recomendable que es leer sino de un sector importante que genera mucho empleo y que está siempre detrás yo como estamos

no voy a hablar de los trece puntos del sailburu de cultura porque evidentemente estamos todos de acuerdo ni tampoco voy a hablar del futuro que el futuro es este plan de fomento voy a hablar del presente porque muchas veces cuando en el parlamento vasco

parece que estamos rellenando un vacío de gobierno poniéndole deberes al gobierno

muchos mimbres individuales y muchas ayudas que son lo que luego se va a resumir

de un plan de lectura pero también está muy bien que digamos cómo está ese plan

pero yo creo que cuando el sector editorial y cuando el sector de los libros toca la puerta al gobierno

ayuda material que evidentemente es lo que quieren y es lo que yo ahora voy a destacar para que veamos cómo

un plan de fomento de lectura sí hay una grandísima activad por parte

con el libro el dos de mayo se aprobó en el consejo de gobierno una orden por la que se regula la concesión de subvenciones para la dotación

que regula para el año dieciocho la concesión de subvenciones para la dotación o renovación de los fondos bibliotecarios integrados el red de lectura pública en euskadi por un importe

también hay que mencionar la línea de subvenciones para la implantación y desarrollo de nuevas tecnologías en bibliotecas públicas con un total de trescientos cincuenta mil euros

dentro de la red de lectura pública vasca además de las cuantías que hemos señalado anteriormente se han abordado también en concepto de comprar de licencias en el año dos mil diecisiete cincuenta y cinco mil euros dentro de la red pública los ayuntamientos que forman parte de esta

seiscientos dieciocho mil para la implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías

al fomento de lectura y por extensión al libro edición librerías y todo el mundo empresarial que cuelga del libro

y los premios literarios de euskadi que como sabemos tiene siete modalidades literatura en euskara literatura en castellano

también hay que indicar que hay una convocatoria de ayudas a la creación grafica para comic y para ilustración

también se le dan ciento diez mil euros a la asociación de la cámara del libro de euskadi

y también veinticinco mil euros anuales a la asociación de escritores de euskadi la asociación de editores en lengua vasca tiene sesenta mil euros anuales la asociación de escritores en lengua vasca tienen otros sesenta y dos el festival de la risa de bilbao que también es literario cuenta con setenta y cinco mil

y también desde instituto etxepare existe una convocatoria de ayudas a la traducción literaria de treinta y nueve mil euros

a audiovisuales música artes escénicas y libros yo con esto lo que quiero es demostrar es que

hay una realidad y esa realidad evidentemente no podemos

a la consejería de cultura que haga con los trece puntos que nos describió el sailburu aquí en el parlamento el once de mayo de este mismo año pero

no inventamos nada nuevo no le damos ningún consejo al gobierno sino simplemente tenemos que

pero que desde el punto de vista formal estaría bien que lo agrupara en un plan de fomento para la lectura y yo de la enmienda que hemos

con el último párrafo que me parece que es muy interesante cuando habla del fomento de la labor social de dinamización de la lectura así como la garantía de las personas con dificultades

como servicios más cercanos y más accesibles a la ciudadanía

derechos como la dependencia o la de los presentes y futuros pensionistas

y empobrecen aún más a las personas más desfavorecidas sin embargo el presupuesto de defensa continua aumentando más del diez por ciento en bi mila hemezortzi

y aumenta por segundo año consecutivo el presupuesto destinado a la casa real

porque aprobar esa subida supone también incrementar su aportación vía cupo nos hablaba el pnv de infraestructuras sanitarias aquel día y esta semana el consejero reclamaba la titularidad de suelos y edificios de varios hospitales pero no hay nada

nos hablaba el pnv de política científica e investigadora aquel día hace meses le recordábamos al señor urkullu que desde dos mil doce desde que

una de esas razones también está en los presupuestos que aprobaron ayer en madrid

a utilizar a través del cdti el centro de desarrollo tecnológico industrial

para el fondo para la investigación científica y el desarrollo tecnológico y la inejecución de la partida de créditos financieros a la investigación

por el reparto competencial esas son cifras que nos repercuten nos repercuten negativamente a las universidades a las empresas

los presupuestos de madrid siempre se inflan y no se ejecutan en partidas que también nos afectan a nosotras

nos hablaba aquel día también el pnv de reclamar la gestión íntegra de las prestaciones y políticas sociales así como la gestión y la competencia de todas las prestaciones subsidios y pensiones no contributivas que gestiona el estado pero tampoco hay nada en lo que aprobaron ayer madrileko aurrekontuak salbatzeko

si el pnv quiere ser creíble con las pensiones acordemos aquí blindar esas pensiones mínimas de mil ochenta euros y la forma de conseguirlo también es sencilla subamos los ingresos

porque según nuestros datos de riqueza si miramos nuestros datos de pib per cápita nos situamos desde luego por encima

que tienen garantizada esta cantidad si ellos pueden nosotros podríamos aprobaron ustedes ayer la subida del salario mínimo interprofesional o la posibilidad de que lo hagamos aquí donde se dan otro tipo de condiciones no verdad los de ayer son unos presupuestos antisociales que asientan la devaluación salarial y la precarización de las condiciones laborales

ni quiere nos hablaba también aquel día el pnv de un pacto social por la inmigración pero ayer aprobaron aumentos para internamiento de personas migrantes en tránsito y disminuyeron los programas de reasentamiento y reubicación de refugiados ante la crisis

esa es la respuesta que aprobaron y que evidentemente también nos afecta el segundo eje que presentaron aquel día era el del empleo la reactivación económica y la sostenibilidad y nos planteaba el pnv responsabilidad y cumplimiento del objetivo de déficit público política fiscal y financiera al servicio del crecimiento y la solidaridad bueno la base de estos presupuestos es la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera nacida de la contrarreforma del artículo ciento treinta y cinco de la constitución

y que supone un recorte de derechos para salvar el sistema financiero este año lo que han aprobado establece un cero por ciento de déficit para nuestros ayuntamientos para todos los ayuntamientos hace falta recordar ya lo que dijeron los ayuntamientos hace falta recordar el informe de eudel lo aprobado ayer vuelve a suponer

la ley de entidades locales que aprobamos conjuntamente saben que no es suficiente ayer lo que se priorizó desde luego no fueron los intereses de los ciudadanos y ciudadanas

lo que aprobaron ayer plantea un aumento de la inversión en el tren de alta velocidad pero si miramos los datos del ejercicio de dos mil diecisiete también de los cuatrocientos millónes de inversiones publicitadas por parte de las empresas públicas para la comunidad autónoma y nafarroa apenas se ejecutaron la mitad es más

porque no llega a ejecutarse el cincuenta por ciento cincuenta y siete por ciento también nos hablaba

qué ha pasado con el plan de mejora de las cercanías que evidentemente también nos afecta cuando lo realmente gastado es muy distinto a lo previsto

tenía cabida ayer nos planteaba el pnv impulsar una economía competitiva baja en carbono

tampoco apuestan por una transición energética no llegan ni al seis por ciento del capítulo correspondiente mantiene el impuesto al sol subvenciona los combustibles fósiles y el

la orden que se publicó en diciembre de tarifas eléctricas desde luego se publicó sin que se eliminara que era la forma en que se iba a producir el ahorro para las empresas vascas

un dato más no solo lo ha anunciado no se cumple sino que los gastos que prevé realizar el gobierno

y nos planteaba el pnv la culminación de las transferencias pendientes del estatuto de gernika

los han votado nos dicen que los han votado

pero han votado a favor de las mismas políticas que supuestamente tenemos que temer dijeron que votar ayer era la mejor forma de que el ciento cincuenta y cinco tenga fecha de caducidad

ataque contra cataluña porque ayer el pnv votó que la mejor manera de evitar las políticas del partido popular y de ciudadanos contra las que defendemos

es votar con el pp y ciudadanos los para que desarrollen esas mismas políticas esto desde luego requiere un máster en metafísica que ni cifuentes hay dos cuestiones una

que no son los que necesita ni los que demanda la sociedad vasca cómo aprueban como partido lo que ese mismo partido luego denuncia desde las instituciones vascas a un techo de gasto impuesto desde madrid a una ley de estabilidad presupuestaria ampliamente contestada a la limitación de la autonomía municipal implantada vía ley de racionalización que les impide responder a las necesidades sociales y que no tiene en cuenta una situación económica mucho más saneada y preparada para asumir la necesaria

hoy se van a quedar otra vez en minoría cuando tenían aquí la oportunidad de articular amplias mayorías cuando tenían allí

articular amplias mayorías a favor de esos derechos que nos dijeron defender en aquel primer

saben perfectamente que ignoran las recomendaciones de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal saben que tienen una previsión que no se va a producir de ingresos

por tanto sus acuerdos tampoco son creíbles aunque esta vez para no ser creíbles el pnv se ha llevado la palma las intenciones centralizadoras del partido popular y ciudadanos son claras y diáfanas lo mismo que sus intenciones antidemocráticas con todos los que defendemos el derecho a decidir

y diáfanos sus acuerdos con upn para no cambiar las políticas de venganza que tiene en estos momentos qué credibilidad

no les han engañado para votar no lo han retirado para que voten decían que su voto es la mejor forma de desactivarlo y también va a ser que no

veremos también qué les dicen los pensionistas y las pensionistas este sábado

dice que valora la estabilidad y llaman estabilidad al austericidio al aumento de la desigualdad le han dado carta blanca a un gobierno

cuando le interesa y que lejos de mantener una relación de igual a igual con nuestras instituciones invade sus competencias vía recursos al tribunal constitucional quitándonos lo que nos corresponde para luego vía negociación y cuando la aritmética parlamentaria no le es favorable

ustedes respondieron ayer a la pregunta de qué tipo de estado español están ayudando a configurar

ayer veintitrés de mayo mariano rajoy y el partido popular estaban pletóricos

el euskadi buru batzar defendía lo indefendible y faltaba a su palabra ayer el partido popular y el pnv aprobaban unos presupuestos generales del estado antisociales que perjudican a la mayoría social en euskadi y en el conjunto

el partido nacionalista vasco ya lo he dicho alguna vez se pasó la campaña electoral diciéndonos que estaba muy lejos de este partido popular que no era posible ni fácil entenderse con ellos nos decía que estaba el partido popular en una deriva recentralizadora

ha cambiado su deriva sus políticas una vez instalados en el gobierno vasco el idilio comenzó y se ha mantenido constante en lo que llevamos

el partido nacionalista vasco ha respaldado al partido popular para que pueda aplicar sus políticas vía presupuestos generales del estado este año lo hacen

de no respaldar esos presupuestos mientras estuviera en vigor el famoso ciento cincuenta y cinco era su línea roja y o yo soy daltónico

para nuestra coalición los presupuestos de mariano rajoy no eran aceptables ni con el ciento cincuenta y cinco ni sin el ciento cincuenta y cinco porque son unos presupuestos antisociales que mantienen todos los parámetros emanados de las recetas neoliberales al servicio del capital

supusieron una drástica reducción de déficit a costa de servicios públicos y derecho sociales el estado de la mano del gobierno del partido popular

de la unión europea algo que no fue una excepción en dos mil diecisiete y que no lo será en dos mil dieciocho

las recetas del capital con los presupuestos para dos mil dieciocho el gobierno se reafirma nuevamente en las mismas prioridades políticas y ya lo dije también en este pleno quien respalda los mismos colabora con estas recetas

la erosión del llamado estado de bienestar derivada de las políticas de recortes en los presupuestos generales del estado durante los últimos años explica en buena medida la situación

el estado de acuerdo a los datos más recientes del eurostat mantiene un déficit estructural con la eurozona en protección social cercano al cinco por ciento

y otro año más partido popular y partido nacionalista vasco aprueban unos presupuestos que lejos de revertir esta situación

en lo referido a las prestaciones del sistema público de pensiones se consolida la no indexación de forma automática y permanente de las actualizaciones al ipc

ignorando además las causas de los problemas del sistema público de pensiones

entre otros el año pasado la aprobación de los presupuestos del partido popular solo fue posible gracias al apoyo del pnv a los mismos algo que los

y como ya dije también una vez ahí está la hemeroteca para comprobarlo el pnv no solo acabó entendiéndose con el partido popular

para resistir en un momento que sin mayoría suficiente en el congreso y asolado por la corrupción brutal de su partido no hubiera podido resistir mucho más un año más tarde estamos ante la misma situación con el agravante de la falta de la palabra dada

el partido nacionalista vasco nos ha bombardeado con que nada de nada de apoyar los presupuestos del pp mientras siguiese en vigor el ciento cincuenta y cinco era su línea roja

montoro cospedal y demás figuras nosotros le preguntamos hace algunas semanas en esta cámara al partido nacionalista vasco qué harían ustedes una vez dejase de aplicarse el articulo ciento cincuenta y cinco sobre el autogobierno catalán le preguntamos

era la única razón por la que se deberían rechazar los presupuestos generales del estado porque para nuestro grupo ya se lo dijimos desde luego no era la única razón a nosotros y a la mayoría de las sociedad vasca nos parece que no era la única razón

nos parece razón suficiente para decir no a esos presupuestos a nuestro grupo la aplicación del ciento cincuenta y cinco también nos parecía un auténtico despropósito ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones pero acaso la ausencia de la aplicación de ese artículo hacía que los presupuestos del partido popular fueran mejores y pudieran ser apoyados pero es que finalmente el partido nacionalista vasco no ha tenido la dignidad de rechazarlos aunque simplemente sea para hacer

los han aprobado con el ciento cincuenta y cinco en marcha los hubieran aprobado con

porque solo era una excusa para poder justificar su respaldo si se retiraba la aplicación del mismo lo cierto en nuestra opinión

nosotros les pedimos que se lo digan abiertamente a la ciudadanía de euskadi comparten modelo económico y social con el partido popular no pasa nada ustedes respaldan ese modelo lo que no nos parece bien

ante los ataques del partido popular también a nuestra sociedad

avalan de manera continuada ustedes

y luego le dicen a los sindicatos que la culpa de no poder respetar los acuerdos de treinta y cinco horas en euskadi es exclusivamente de madrid que nada tiene que ver esto con ustedes

eso sí una de las políticas de gasto que se incrementa de manera notable en estos presupuestos de nuevo es la del gasto en defensa

se retrasa la equiparación de la jubilación para las trabajadoras del hogar una medida de la que también van a ser cómplices y que va en contra de lo que solemos decir aquí de la necesidad de la igualdad real también

y mujeres además ya se ha dicho desde luego son unos presupuestos que aumentan las dotaciones para monarquía para la iglesia etcétera

son en nuestra opinión dramáticas y apoyar esos presupuestos es apoyar esas decisiones el partido nacionalista vasco

marca no exclusiva del partido popular pero que parece que sí han patentado ellos el partido que diseña estos presupuestos y ni tan siquiera hace falta referirse a eduardo zaplana

el número dos en el diseño precisamente de estos presupuestos acaba de ser llamado a declarar como investigado por supuestos delitos de prevaricación continuada malversación de caudales públicos cohecho y tráfico de influencias respaldar estos presupuestos

nosotros pensamos que debemos rechazar desde el parlamento vasco unos presupuestos al servicio de las élites

pensamos que esa es la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca y por eso pensamos que así debe ser recogido también en este pleno con la votación de hoy nosotros le décimos al partido nacionalista vasco ustedes sigan respaldando al partido popular

legítima pero luego no le vendan a nuestro pueblo una falsa confrontación con los de mariano rajoy

socioeconómico tal vez con distinta bandera pero el mismo modelo socioeconómico por eso nosotros pensamos que en realidad no les ha costado nada llegar a un acuerdo

ustedes respaldan los presupuestos porque era la única opción que valoraban porque son unos presupuestos que a ustedes

porque les sirven para que se aplique un modelo socioeconómico que comparten en el conjunto del estado y también en euskadi y porque les sirve también para que en madrid se aprueben recortes que luego ustedes venden aquí como que vienen solo de madrid con los que no tienen ustedes y por lo tanto le dicen a la sociedad vasca que ustedes no tienen la culpa de los recortes que se aplican en euskadi ustedes son cómplices de todas estas políticas y a nosotros nos parece muy bien que el parlamento vasco diga claramente que estos presupuesto generales del estado

consejero señorías buenos días hoy los socialistas reiteramos la posición que mantuvimos y expresamos hace un mes de rechazo a unas cuentas generales del estado para el dos mil dieciocho

y que además renuncian a impulsar medidas que garanticen la calidad en el empleo el blindaje de los servicios públicos y de los derechos sociales y también renuncian a un nuevo modelo económico rechazamos los presupuestos generales del estado también por coherencia con el acuerdo aquí refrendado hace hoy un año y siete días

un acuerdo defendido por los socialistas y que obtuvo el respaldo mayoritario de esta cámara hoy vamos a hablar de los contenidos presupuestarios y de las razones de nuestro rechazo a esos presupuestos

lo podemos confirmar para algunos grupos la justificación de este debate

a unos acuerdos que los partidos adoptan entre ellos

debemos aceptar porque son legítimos aquí no es raro que el grupo proponente hoy de la iniciativa pacte en esta cámara con el partido popular determinados asuntos

de la iniciativa de hoy pacte con el pnv posiciones de máximos nacionalistas y en uno u otro caso siempre hay argumentos siempre se encuentran

y ya puestos nosotros no dejaremos de recordar que hace dos años hubo una oportunidad en madrid de abrir el camino a un proyecto alternativo para gobernar españa y que a excepción del grupo socialista todos los partido aquí representados

y se prefirió optar por mantener la vía ya conocida de rajoy hay quienes han reconocido en público que aquello fue un error y no se trata de que aquí hoy nadie se flagele pero permítannos a los socialistas que digamos que de aquellos polvos estos lodos

el del rechazo al proyecto presupuestario del gobierno de rajoy para dos mil dieciocho es también consecuencia de aquella decisión y de todos los grupos parlamentarios vascos

unos antes que otros es verdad y que finalizó en el día de ayer el partido socialista obrero español ha mantenido su posición de enmendar a la totalidad el presupuesto para dos mil dieciocho teniendo en cuenta exclusivamente el interés común del conjunto de la ciudadanía española

un rechazo en función de los intereses de los independentistas catalanes antes y después de torra de su designación y de sus decisiones

porque se han utilizado como una mercancía en la negociación política

hasta el momento de la enmienda presentada por el partido socialista obrero español en el congreso

en el pacto de estado sobre la violencia de género y porque son unas cuentas que se olvidan de la recuperación social del país sin la cual nunca podremos considerar que hemos salido de la crisis el partido socialista obrero español y los socialistas vascos defendemos desde el respeto a las singularidades

los y las socialistas vascas no entendemos el progreso de euskadi sin compartirlo con el progreso de otros pueblos cada comunidad autónoma

pero con el objetivo compartido de un proyecto común y estos presupuestos perjudican a ese proyecto común porque no impulsan

en la pluralidad del estado un proyecto común que necesita además una recuperación sin más dilación de los grandes pactos sobre los que se sustenta un estado social

los derechos laborales que se abolieron hace siete años necesita volver a garantizar el derecho a la salud universal que fue laminado con el medicamentazo hace seis años necesita recuperar los grandes consensos sobre el sistema público de pensiones que fueron derogados por decreto hace cinco años necesita poner en primer plano a las mujeres a su plena libertad

con diferentes normas impuestas en la época de la mayoría absoluta se nos han acumulado las razones para rechazar estos presupuestos

y nos sentimos también chantajeados se ha constatado en estos últimos meses que el gobierno de rajoy ha secuestrado la demanda de nueve millónes de pensionistas en españa y de medio millón de pensionistas en euskad alegando falta de recursos

y de mil ochocientos millónes de euros para actualizarlas en dos mil diecinueve que de forma mágica

esos recursos aunque con la habitual transparencia del partido popular nadie explica ni a los pensionistas ni a la ciudadanía de dónde van a obtenerse esos recursos porque con la tributación de las grandes empresas tecnológicas que parece que es lo que plantea el partido popular para conseguir recursos en el pacto de toledo siguen faltando

y también tienen les ha afeado la comisión europea que superan el límite de déficit nadie ha explicado cómo de repente ha sido posible

del congreso de los diputados pero lo más grave para los socialistas no es que el pp no se crea o no crea en el sistema público de pensiones lo peor se esfuerza en demostrarlo pone empeño en demostrarlo y pone de manifiesto en cualquier ocasión que se tercie

de la tercera edad y por eso repetimos el futuro del sistema público de las pensiones en españa no depende del futuro de los presupuestos generales ni del futuro de rajoy

por la mayoría absoluta del partido popular porque si el marco normativo se mantiene de aquí a dos mil veintitrés los pensionistas perderán el once por ciento de su poder adquisitivo el futuro de unas pensiones dignas depende de derogar la desactualización de los incrementos en un cero coma veinticinco por ciento

no en dos años y de vincularlas al ipc que es lo que establecía la ley en un principio una ley que había sido acordada entre diferentes partidos en la etapa anterior el futuro de unas pensiones dignas depende de la derogación del factor de sostenibilidad inventado para cargarse el sistema público de pensiones y favorecer así un sistema privado de ahorro

dual de jubilación el de pensionistas en su minoría con posibles

en su mayoría pobres estos presupuestos dejan a españa como el país más desigual de europa un país donde el veinte por ciento que tiene más rentas posee siete veces más que el veinte por ciento que menos renta tienen

del treinta y ocho por ciento la españa en la que el gasto social y productivo vaya cayendo hasta ese treinta y ocho por ciento los presupuestos no asumen ninguna derogación ni cambio ni modificación de la reforma laboral proponen un estado social

y rechazamos estos presupuestos también por solidaridad con otros pueblos de españa cuyo autogobierno no les permite realizar acciones como las que tenemos establecidas en euskadi

cuando nos ocupamos de garantizar el derecho a la vivienda

para quienes no tienen ingresos en euskadi asumimos nuestras responsabilidades ejecutando nuestra capacidad competencial se trata de que el gobierno de rajoy asuma las suyas de una vez y en estos presupuestos no lo hace y no lo hace porque no se ha creído nunca lo del estado del bienestar

tenían un plan para desmantelar uno de los pilares del estado del bienestar el de la sanidad pública la educación pública los servicios sociales y la seguridad social principalmente las pensiones públicas y tampoco tienen un proyecto de futuro como demuestra su cicatería

en investigación e innovación y los socialistas entendemos que esta estrategia contra el estado de bienestar y la falta de un proyecto de futuro es lo que reflejan estas cuentas

que ninguna de las mejoras económicas que nos publicitan se traducen en mejoras para la mayoría de la población

y para euskadi han tenido lugar cuando se ha impulsado el crecimiento económico sí pero también simultáneamente

justo de ese crecimiento económico y como creemos que eso no ocurre con los presupuestos generales del estado es por lo que no los apoyamos esta es una posición la del psoe y la de los socialistas vascos una posición que teníamos

anunciara los presupuestos para dos mil dieciocho el gobierno del señor rajoy el gobierno del partido popular no nos ha dado a los socialistas ni un solo motivo para cambiar esa posición y es una decisión que tomamos sin tener que esperar a que lo decidiera
el señor puigdemont nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera anderea

yo no sé si este es un debate absurdo o no pero por recordarles a ustedes

que vengan a decirnos que ustedes votaban en contra o estaban en desacuerdo ya lo sabíamos puedo entender

no les haya gustado la intervención de sus portavoces en el congreso piensen que ellos lo podían haber hecho mejor y entonces nos traen hoy aquí este punto para demostrarnos porqué se oponían

en cualquier caso yo sí quiero decir algunas cositas los presupuestos que se aprobaron ayer

a la negociación y a la recuperación económica conseguida pese a los tres grupos que han intervenido antes en esta tribuna y son unos presupuestos

que son los más sociales que ha tenido un gobierno de españa nunca

que son unos presupuestos que mejoran las pensiones que amplían el permiso de paternidad

que mejoran los salarios que incrementa la financiación de las comunidades autónomas aquellas donde ustedes gobiernan

y no les he oído decir nada y que incrementa las inversiones un diecisiete por ciento

es un presupuesto que responde decía a acuerdos responde al acuerdo con los agentes sociales y los sindicatos de funcionarios y recoge las subidas que se acordaron allí recoge el acuerdo del pacto de estado con todos estos grupos que tanto dicen que

y dota contra la violencia de género en más de los doscientos millónes previstos más

se lo digo a usted porque es que sigue repitiendo que falta ese dinero más de los doscientos millónes previstos responde al pacto con las comunidades autónomas donde gobiernan psoe podemos y ciudadanos y se incrementa la financiación de las comunidades autónomas en más de cuatro mil millónes de euros que no es poco

entre siete partidos políticos diferentes por lo tanto es un presupuesto en el que ha trabajado ha colaborado

en el que se han aprobado más de doscientos sesenta enmiendas en el trámite de enmiendas en el congreso de los diputados de muchos grupos

es un presupuesto que responde a acuerdos lo cual por cierto muestra que el señor rajoy

para negociar con sindicatos con todos los grupos del congreso con las comunidades autónomas y con otros seis partidos algo digo yo que habrá hecho

dice usted no revierte en las reformas a ver las leyes de presupuestos

presenten ustedes la modificación de las reformas que quieran en el congreso de los diputados pueden hacerlo no modifica el modelo de crecimiento económico cómo que no lo modifica esta ley de presupuestos no todas las reformas anteriores sí o no se acuerda usted cuál era el modelo de crecimiento en la época del partido socialista no era el de la vivienda

no se fue todo al traste precisamente por eso cuál es el modelo de crecimiento de españa en los últimos años no no cuál es el de la vivienda no no

el de las exportaciones fíjese si ha cambiado el modelo de crecimiento y fíjese si se ha creado empleo y si seguimos un poco más unos años más superaremos los veinte millónes de trabajadores

jamás ha habido tantas mujeres trabajando como lo están haciendo hoy casualmente gobernando el partido popular no el partido socialista qué quiere que le diga son datos

son datos y hombre yo creo que le moleste mucho lo de las pensiones

suben las pensiones pero es un engaño las pensiones y no nos dicen de dónde sale el dinero

haber estado usted en el congreso de los diputados a lo mejor

al señor montoro cuando dio estos datos el lunes el lunes pasado

a todos los grupos que estaban allí que cuando se aprobó el techo de gasto el año pasado la previsión de recaudación era

aunque los datos no eran oficiales pero ya se los adelantaban a ustedes

se estaba incrementando la recaudación en más de seis coma siete por ciento

que el incremento era de un quince por ciento en los cuatro primeros meses de este año

ocultismo de las cuentas y que no se explica de dónde sale el dinero sí sí se explica pero hay que querer escuchar oír

y ya lo de los pensionistas y el poder adquisitivo mire los pensionistas en españa

gobernando el partido socialista obrero español que congeló las pensiones teniendo el fondo lleno

y fue una decisión política para cuadrar con el dinero de las pensiones otros gastos

sí sí porque desde que está gobernando el partido popular no han perdido ni un solo año el poder adquisitivo se ha incrementado

que aquí hay partidos que les gustaría que cuanto peor fueran las cosas pues mejor para ellos siento que les moleste que las pensiones más bajas vayan a subir un tres por ciento siento que le moleste mucho que las pensiones

ya lo siento ya sé que ustedes hubieran preferido que no subieran nada para poder echar en cara al partido popular lo que hace

pues mira hacemos lo contrario de lo que hacían ustedes ya ve suben las pensiones se garantizan

y luego nos viene diciendo que es que teníamos un plan para desmantelar el estado de bienestar social la sanidad la educación pues no sé

casualmente jamás nunca se ha gastado en españa tanto en sanidad jamás nunca se ha gastado tanto en educación

que los españoles lo saben porque cada vez que ustedes gobiernan y llevan al país al borde de la ruina llaman al partido popular para que lo solucione

porque saben quién gestiona bien y quién saca las castañas del fuego y quiénes son unos manirrotos creo que les llegó a llamar en algún momento el señor montoro ese chiquitín que por lo visto oculta los datos

pero podían prestarle un poco de atención porque además a lo mejor así aprendían algo siento decepcionarles pero los funcionarios van a cobrar más ya sé que les gustaría que se congelaran la subida de los sueldos de los funcionarios

porque creo que ustedes gobiernan en el gobierno vasco aunque no veo ninguno de los consejeros socialistas verdad van a poder aplicar esa subida salarial a los funcionarios del país vasco porque hay estos presupuestos porque si no no lo podría hacer y usted debería estar contenta

que los que votan en contra en realidad están contentos de que haya presupuestos y algunos de los que han votado a favor yo les veía ayer salir del congreso y tenían una cara que parecía un funeral pero bueno son las paradojas que la política está produciendo en estos días no y vemos extraños raros contrapuestos y estamos en un momento económico saliendo poco a poco de la crisis en la que estábamos vamos bien españa y el país vasco pero corremos riesgos porque la estabilidad

tiene que ser política porque si no hay estabilidad política

evidentemente se resienten y está muy bien apoyar los presupuestos del gobierno de españa porque son buenos

en riesgo el modelo de crecimiento y la estabilidad otros acuerdos que se producen en este parlamento en concreto en una ponencia denominada de autogobierno

bai eskerrik asko señor damborenea yo cuando usted sale tomo notas además sobre todo en la parte que tiene que ver con las amenazas o avisos permanentes que le dedica aquí al partido nacionalista vasco

hablando y hablaba también sobre que no iban a aprobar los presupuestos con el ciento cincuenta y cinco y el aviso que le dio a alfonso alonso

al tiempo el tiempo desde luego le ha dado la razón al señor alfonso alonso las cosas como son sin embargo también el partido popular entre lo que dice

hoy acabamos de conocer que se acaba de hacer partícipe al partido popular en grado lucrativo por la caja b

es a qué se le da preferencia a cumplir la palabra

pueblo a pueblo todo lo que han conseguido y les van a contar todo lo que no han conseguido también van a contar las dos cosas

precisamente yo aquí en los quince minutos que he tenido de exposición precisamente he comparado lo que el pnv dijo para esta legislatura no para otras y todo lo que no se ha conseguido en ese acuerdo del pnv

todo lo que no porque cuando usted decía también hemen ez dutela eraginik izango hori bai

bueno ya explicará desde luego lo que ha querido decir con eso

desde luego no es un simple hecho administrativo de menor trascendencia y en eso creo que estamos de acuerdo es algo que ha hecho el partido popular con acuerdo de ciudadanos y el psoe y también con la complicidad de determinados aparatos del estado

un gobierno y parlamento legítimamente elegido y constituido intervenir y dominar presupuestos eliminar políticas y proyectos cuál va a ser el coste también

en cataluña les van a dar un cálculo de lo está suponiendo el ciento cincuenta y cinco a cataluña

y esa es la parte que veníamos a contar aquí cuando ustedes han aprobado unos presupuestos que son malos cuando dicen que han conseguido cosas hay una parte que necesariamente el estado tiene que dar a todas las comunidades autónomas y en lo que nosotros nos corresponde hay una parte de infraestructuras

este tipo de financiaciones al resto de comunidades salvo que se acuerde así es algo que se corresponde y que tiene que ir incorporarse y ustedes vuelven a llegar a un acuerdo en minoría

una minoría además con un partido un partido que es una amenaza permanente para todo lo que queremos desarrollar aquí

cuando usted ha planteado como yo le he planteado lo que este gobierno el gobierno vasco junto con el gobierno de nafarroa había planteado al gobierno de madrid y sabe que están votando

les estoy diciendo lo que ustedes han propuesto no lo que les hemos dicho nadie sino lo que

dijeron que se quería hacer y lo que ellos han dicho son lo que ustedes han votado al cerrarle la puerta eso es lo que le he dicho esa es la condición que había puesto upn para los presupuestos

es apoyar que efectivamente rajoy no haga absolutamente nada están en minoría es un mal acuerdo no cumple la palabra

claro que nos afectan y de qué manera nosotros ya hemos dicho alguna vez ya se lo hemos dicho alguna vez al partido nacionalista vasco los presupuestos generales del estado nos guste más o menos

a la vez decirnos a las ciudadanas y ciudadanos de euskadi que ustedes aprueban unos presupuestos porque supuestamente

que ha conseguido el partido nacionalista vasco en una negociación de la que ya nos enseñará punto por punto

y a la vez decirnos que eso es una cosa de madrid que no es algo estrictamente

una contradicción nosotros seguimos defendiendo que los presupuestos generales del estado también son agenda vasca y que nos preocupa de ellos

a las ciudadanas y ciudadanos de euskadi y que también nos preocupa de ellos cómo afectan

del estado español nos preocupa y es verdad

señor damborenea que algunos grupos hemos aprovechado el debate para hacer reproches

para hacer reproches sobre los acuerdos a los que se ha llegado claro claro si nosotros no estamos de acuerdo con esos presupuestos y nos parecen como hemos dicho anti sociales y nos parecen negativos

y más cuando esos acuerdos firmados con el partido popular uno de los firmantes es

del gobierno vasco y el partido vasco con mayor número de votos con mayor presencia en esta cámara claro que venimos a reprocharles eso

nos parece absolutamente legítimo que esta cámara se posicione sobre este tipo de cuestiones

que es la opinión mayoritaria de la sociedad vasca que rechaza ese acuerdo porque posibilita unos presupuestos generales con los que mayoritariamente no estamos

elkarrekin podemos ni siquiera ha planteado su objeción a los presupuestos

en base a que estuviera en aplicación el ciento cincuenta y cinco claro que no es que hemos ido más allí

y lo hemos dicho desde el principio ni con el ciento cincuenta y cinco ni sin el ciento cincuenta y cinco nosotros no hemos estado nunca de acuerdo con la aplicación

ustedes bien pero nosotros lo que hemos dicho y constantemente además también en esta cámara es que los presupuestos del partido popular a nosotros no nos gustan no estamos de acuerdo con ellos son antisociales y por lo tanto nosotros pensamos que hay que rechazarlos

en aplicación y nosotros pensamos sinceramente que el tema de subir las pensiones al ipc en dos años es un auténtico engaño para la sociedad

y no me vale salir con el acuerdo del uno de marzo donde uno de los puntos efectivamente era que las

porque eso es lo que han aprovechado ustedes y ellos para subirlas dos años

y además con otros elementos y por lo tanto a nosotros eso nos parece bastante mal y que es un engaño a la gente y además seguramente va a implicar otra cosa

qué va a pasar con el fondo de reserva porque también en ese acuerdo del uno de marzo se hacía alusión a que se debería acabar con la utilización

a nosotros nos parece como dije antes que el partido nacionalista vasco apoya estos presupuestos

políticos o cree él que le van a dar unos réditos políticos no porque vaya a conseguir algo para él en el sentido de que le van a dar algo al partido nacionalista vasco ya sabemos

de la sede en bilbao porque además seguramente no lo necesitan pero nosotros pensamos que esto a ustedes les permite primero que se aprueben unos presupuestos que van a un modelo socioeconómico que ustedes comparten y por lo tanto que para ustedes no les genera ningún problema ni contradicción en segundo lugar

una serie de recortes y limitaciones que luego nos van a afectar en euskadi y que cuando vengan aquí ustedes dirán y les dirán por ejemplo a los sindicatos que la culpa es de madrid que la culpa es del estado español muy bien

de esas limitaciones que se aprueban en el conjunto del estado que se aprueban en el congreso de los diputados yo he puesto el ejemplo

y yo les decía ya esto se va a aprobar nuevamente esta tarde en los presupuestos generales del estado

y luego les dirán a los sindicatos cuando vienen a comparecer como ya lo han hecho en más de una ocasión

y es cierto madrid y el partido popular se lo impiden pero con su apoyo y con su colaboración y lo mismo pasa les dirán lo mismo a las trabajadoras de hogar

a decir qué ha pasado con la equiparación de las pensiones que se alarga cinco años más allá en el tiempo

nos dirá que este es un debate que no tienen que traer ustedes a esta cámara porque es una cosa de madrid

a nosotros nos parece ser coparticipes de esas políticas y por eso

en esta cámara por el hecho de ser ciudadanos ciudadanas vascas y españolas también señor damborenea y estamos en contra que las pensiones sean unas de las mercancías en la negociación política mire decía

en dos mil trece dijimos que las pensiones no deberían subir en función del ipc y lo creo y lo creo y usted señor damborenea está haciendo trampas porque sabe perfectamente que el tema de las pensiones y su revalorización y actualización no es cierto los datos que ha dado usted

para los cónyuges con cargo perdón con cónyuge a cargo y un treinta y seis por ciento para quienes no lo tenían

las pensiones mínimas ganaron poder adquisitivo y superaron veintiocho y trece puntos porcentuales respectivamente al índice de precios en el periodo anterior a dos mil cuatro durante los dos mandatos de aznar las pensiones mínimas de jubilación crecieron un tres coma siete por ciento

popular con una media de cada año apenas siete décimas más que el ipc de promedio mientras que con el partido socialista obrero español se incrementaron en promedio hasta casi

en función con cónyuge a cargo y un cinco por ciento para los que no lo tenían en el periodo posterior a dos mil once durante los gobiernos de rajoy como se han fundido ustedes las huchas de las pensiones que ya tiene cuajo decir lo que ha dicho usted de que nos hemos fundido la hucha de las pensiones si se la dejamos con setenta y seis mil millónes de euros

nosotros hemos vaciado la hucha de las pensiones vamos señor damborenea por favor a ver si nos ponemos un poquito las pilas y décimos las cosas al menos

los socialistas vascos lo que estamos en contra señor damborenea de los presupuestos generales del estado para dos mil dieciocho concretamente con lo que plantean ustedes de crecimiento económico

en el tema de suprimir la cesión del diez por ciento de suelos para los ayuntamientos estamos en contra de la burbuja inmobiliaria que también fue cosa suya esa mochila no la llevamos nosotros la llevan ustedes si no me haga gestos porque es que es así todos tenemos memoria

es lo que tiene que a una le van haciendo también un poquito de historia estos presupuestos señor damborenea son los menos sociales desde el año

con el índice de precios al consumo en el tema de la prioridad de gasto y su peso en los presupuestos si los compara usted en términos de precios o en términos también de renta nacional o de producto interior bruto como quiera compararlos estos presupuestos son los menos sociales desde el año dos mil nueve

en el incremento de la desigualdad para ser competitivos el crecimiento económico y la competitividad se financian siempre por la vía de la desigualdad

del dos mil dieciocho el pib fíjese señor damborenea que se va recuperando desde hace diez años sin embargo los servicios públicos no se recuperan en los presupuestos generales del estado para el partido popular el crecimiento económico solo es posible con más desigualdad lo que rajoy montoro y el pp llaman despilfarro y borrachera de gasto público los socialistas lo que llamamos

inclusivo un crecimiento inclusivo necesario para tener un país digno y para que haya dignidad de país y justicia social hace falta también justicia

ni garantizan la justicia fiscal ni la promueven el partido popular sigue planteando aquel famoso dicho de cuanto peor y lo que es más grave lo que decía el señor rajoy el trece de junio de dos mil diecisiete cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos

y el suyo beneficio político tal cual se lo leo yo saco dos conclusiones de este debate una

han condicionado una negociación presupuestaria con el artículo ciento cincuenta y cinco de la constitución española se han metido en un jardín del que han salido trasquilados porque ni han conseguido levantar la aplicación del ciento cincuenta y cinco y sin embargo

en defender los intereses de españa y de su ciudadanía uno con la enmienda

y yo lamento lamento que estos presupuestos supongan que no se van a corregir las políticas antisociales que lleva planteando el pp

muchos años y lo que es peor que se sigue consolidando la desigualdad en españa y en euskadi nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera

señora larrion nosotros no amenazamos no lo hemos hecho nunca ahora puedo entender que

y sabe mejor que yo de lo que habla no me diga que hay cosas que tienen que incorporarse obligatoriamente en los presupuestos porque sí pero si no se aprueban no están

tenían que estar incluidas pero si no hay presupuestos pues no hay presupuestos

si es lo que pactaron el otro día sí amenaza permanente no garantía de que no se va a llevar a cabo eso es lo que somos

y eh bildu nunca llegue a efecto aplicando las normas las leyes que es el fundamento de la democracia a

elkarrekin podemos nos dice que lo de las pensiones y el ipc es un engaño

cobren la pensión pues veremos si es un engaño la subida o es un engaño su discurso

siete años llevaba gobernando sabe por qué no gobernó el octavo

y aquí dejó el pastel por qué adelantó las elecciones

y lo que usted llama crecimiento cómo he dicho inducido en vez de despilfarro económico

fueron un despilfarro tras despilfarro tras despilfarro incluido lo que se dio a los ayuntamientos fue un despilfarro

otro despilfarro le estalló al séptimo año

y convocó elecciones porque no sabía qué hacer los socialistas

pues llevaron al caos al país y se fueron

de por qué están en contra de estos presupuestos porque en su primera intervención usted me ha dicho que antes de que los hubieran presentado el señor montoro ya estaban en contra por lo tanto

es más ustedes han perdido una oportunidad delante de todos los españoles de poder hacer las cosas bien de poder negociar sentarse a negociar señora corcuera sí a negociar aunque solo sea para abstenerse

algo con lo que poder presentarse ustedes en las siguientes elecciones ante los españoles

parte del no no has entendido y yo no me siento a negociar

sin leerlo a ver es una forma política de actuar que es la que están haciendo ustedes pero claro yo no le he dicho que vaciaron la hucha de las pensiones yo lo que le he dicho es que a pesar de que la hucha estaba

con las subidas congelaron las pensiones ese año

más de tres puntos y con la hucha llena por qué porque para cuadrar las malas cuentas había que utilizar el dinero de las pensiones para otras cosas sí
sí lo saben tan bien como yo isiltasuna mesedez y señor egibar

yo entiendo que cada partido tiene sus esquizofrenias pero le voy a recordar que con nosotros ya pactaron los presupuestos de este gobierno vasco estos que están vigentes

que tan malo le parece pactar con el partido popular pues creo que hemos pactado con ustedes los presupuestos que están gestionando desde el gobierno vasco

estos presupuestos que tenemos aquí son muy sociales o son muy anti sociales qué son porque están pactados con nosotros señora corcuera claro

los súper de izquierdas que son súper sociales

intervenida una expropiación política institucional con la gravedad que tiene con una doble estrategia la estrategia política marcada por el ciento cincuenta y cinco que establece los límites no solo para cataluña sino también para euskadi establece los límites

y hay una estrategia penal que pretende que toda una generación de dirigentes nacionalistas o soberanistas termine en la cárcel ese es el ciento cincuenta y cinco y si tenemos que quemarnos nos quemaremos y hemos hablado de lo que ha sido nuestro nivel de responsabilidad en el tema

en este declive de las abejas e insectos polinizadores desde el ámbito científico se señalan como causas

el uso de ciertos pesticidas y las prácticas de la agricultura intensiva la extensión de especies invasoras como la avispa asiática o los efectos cada vez más notorios del cambio climático

por todo ello uno el parlamento vasco reconoce el papel esencial de las abejas y de otros insectos polinizadores como mariposas y abejorros